legebiltzarkideok egun on denoi en mi corta estancia en este parlamento ahora va a hacer un año es la primera vez

es obvia podría ser una tontería pero no voy a faltar a la cortesía parlamentaria y además señora garrido para preguntar una obviedad ha agotado todo su tiempo me he quedado alucinado los quince minuticos uno tras otro y ahora claro se han apuntado todos a la juerga

una pnl que usted presenta que dice que el consejero de salud venga aquí

hacemos comidas cenas lunches para celebrar nuestro deseo va usted y nos lo estropea planteando esta pnl que

y menos sustanciarse en un pleno y en última instancia debería de haberse retirado

y hay comisiones parlamentarias lugar propio para tratar lo que usted trae al pleno

luego hubo preguntas respuestas se contestó a todo lo que se pidió tras las vacaciones de verano

merecidas para unos sí y para otros no eso cada uno que se quede con lo que quiera se firmó un pacto entre partido socialista y pnv eso todo el mundo lo sabe es público

el once de octubre el señor consejero le responde que previsiblemente en octubre

y que el plan director probablemente en enero de dos mil catorce sabido por la señora garrido

a la comisión de salud el plan funcional famoso el dieciocho de octubre presenta

que el consejero presentará el plan funcional ante la comisión de salud y consumo lo que hoy hacemos como que debatimos porque están sacando

en este caso utilizando la herramienta parlamentaria apropiada para el caso solicitó la presencia en la comisión del consejero para explicar qué

el día veintinueve de octubre se citó a la comisión de salud y consumo de este parlamento en la sede del gobierno

se nos presentó el plan este y se nos pidieron opiniones y alegaciones por cierto ningún grupo ha presentado

y además acudieron representantes de todos los grupos parlamentarios menos upyd supongo que está tan ocupado que el hombre no llega a todo escuchamos

el treinta de octubre un día después exactamente un día después

urgente repito comparecencia urgente ante la comisión para explicar el plan funcional

que no es porque el consejero de salud no halla mostrado su voluntad de venir

y es cuando se le dijo que ya no había tiempo de aquí a navidades por las fechas en las que estamos y por las agendas ocupadas y se ha quedado el primer día

hasta aquí la carrera de acontecimientos al menos los formales

a mí me resulta básico tomar posición política es lo mínimo que se puede pedir

y en la medida de lo posible intelectualizar sobre el mismo si al tiempo lo trufo de algunas citas

nos hemos definido hemos aprendido y si en alguno fuera posible nos hemos enriquecido intelectualmente

el caso que nos trae aquí la posición es obvia se ha solicitado la comparecencia por un grupo y el propio consejero la ha solicitado con carácter urgente pues

que sí que venga que todos tenemos ganas empezando por el propio consejero a partir de ahí en un intento de aportar algo más

incluso en algunos momentos la desazón a qué viene mantener esta pnl cuando no resulta necesaria cuando lo que pide ya está logrado

está concedido qué aviesa intención tiene quien persiste en lo obvio

que esta es una isla rodeada de agua además de una tontería está señalando una obviedad y una redundancia si el consejero ha pedido venir aquí para explicar una cosa a qué nos reunimos todos para acordar que ese señor consejero venga si él ya ha dicho que quiere venir

pudiera tener sentido que alguien molesto por lo que sea solicitase en una pnl

en tanto en su día les fue negado cuestión a la que yo por cierto

podría ser un intento político de baratillo para descubrir públicamente que el consejero no quiere venir a explicar algo que usted presupone le resulta molesto pues no

el consejero quiere venir a explicar algo sobre lo que ha trabajado con intensidad e inteligencia se lo ha explicado a médicos enfermeras personal subalterno celadores de hospitales y a la comisión de salud del parlamento vasco también en la sede del gobierno vasco

pidió venir con urgencia aquí por si acaso que quede claro y público pidió venir a la comisión hace mes y medio de él no depende

él lo solicita otra cosa es que aquí se aproveche para decir que se cambió el plan funcional porque vinieron unos jefes de servicio vinieron unos y no

podemos debatir todo lo que usted quiera pero yo vengo a debatir la pnl que usted ha propuesto

si le voy a votar que sí cómo le voy a votar que no y va a salir usted

y además ha ganado por unanimidad bravo y todos los demás perdiendo el tiempo

perfecto en cualquier caso el tema no merecería ni una frase

que decía la tontería es infinitamente más fascinante que la inteligencia

sí señor tellería pero le iba a decir que no ofende quien quiere sino quien puede yo creo que es obvio que usted

que votar a favor de esta iniciativa no iba a salir pero viendo su intervención que me ha parecido

claro que este grupo y esta parlamentaria ha hecho un repaso del proyecto del

porque este grupo es que ha apoyado este proyecto y lo sigue apoyando lo que está claro es que el partido nacionalista ni lo apoyó la pasada legislatura

y por eso nos presenta un plan funcional de treinta y cinco páginas en mayo

que por cierto solicitamos la comparecencia la solicita también el consejero ni vino y como también se ha dicho aquí lo ha señalado la señora ubera

como sabíamos también que había sido presentado en las dos sedes a los distintos profesionales

nos hicimos con ese plan pero no fue remitido al parlamento hasta que compareció el consejero y esta parlamentaria sí solicitó la comparecencia pero visto que dicha comparecencia no tuvo mucho éxito porque ni vino el consejero a comparecer como usted bien recordará porque vino el viceconsejero y el director de asistencia sanitaria esta vez

adecuado y oportuno y lamento que al partido nacionalista vasco y a usted concretamente le haya molestado tanto esta parte está

que se remita ese plan funcional ese plan funcional que efectivamente si lo tengo aquí porque estuvo en la reunión a la que usted ha hecho referencia

actualización del plan funcional para la reforma del hospital universitario de álava estado de situación pero es que lo que queremos saber

el estado de situación de este plan funcional a día de hoy o a día de los meses posteriores a los que nos fue presentado porque como el primero fue modificado y fue modificado por las críticas y porque fue cuestionado y ustedes lo saben porque sino hubieran mantenido ese plan funcional

parece ser porque como no lo conocemos lo que hemos tenido ocasión de conseguir o de tener en esa reunión que todavía no sabemos además si es lo definitivo y aparte de las fechas

ustedes nos llaman el veintinueve de octubre qué casualidad nos llaman el veintinueve de octubre a una reunión informal

el treinta de octubre y lo que me parece ya sabiendo

es desde luego cargar intentar cargar las culpas

sabe las convocatorias de la comisión de sanidad que hemos tenido en el último trimestre y si no es una por semana pues prácticamente

como va a comparecer el consejero desde este grupo lo que queremos para economizar y para optimizar el tiempo a eso como usted hacía referencia no perder el tiempo

este el que tiene ahora en sus manos que nos lo dé si se ha modificado que nos lo remita al parlamento que es el sitio al que tiene que remitir el parlamento a mí me da la sensación y me remito a los calificativos que se han vertido en esta

se habla de improvisación se habla de indefinición se habla de retraso

de que este ejecutivo el tema del hua como que no va mucho con él y que como

pues sí ya hizo las primeras manifestaciones el señor urtaran si el señor urtaran les quería marcar el paso

absolutamente desafortunadas un portavoz municipal que no sé qué hacía opinando del plan funcional al principio de la legislatura cuando ni había tomado posesión el nuevo gobierno me da la sensación de que ustedes esto de la sanidad en álava no sé si un poquito de refilón yo espero en cualquier caso

que se merece y espero que ustedes en la comparecencia y antes

que este proyecto le interesa a este gobierno eskerrik asko garrido andrea

para decirle al señor tellería que muy inteligentemente ha presentado

para solicitar la comparecencia del consejero mientras que

activo el consejero ha pedido comparecencia oiga dice urgente

con fricción pero si no existe eso en el reglamento del parlamento

existe solo la comparecencia y en primer lugar y en segundo lugar le voy a señalar que

la responsabilidad no puede ser del presidente de la comisión de salud que como usted sabe es precisamente

y que gestiona precisamente toda la actividad de la comisión de salud con muchísima diligencia además

con el consejero con el consejero nos hemos reunido informalmente miembros de la comisión de salud en absoluto consideramos eso una reunión de comisión de salud formal de hecho

pedimos la comparecencia del consejero en el parlamento este grupo parlamentario para precisamente hacer la reunión formal y taquígrafos no una reunión cerrada en lakua no una reunión todo lo informal y lo estupenda que pudiera ser y la información que se nos facilitó esa no es una actividad de la comisión de salud

y eso es lo que pedimos comparecencia del señor consejero en este parlamento es más mire usted

de las solicitudes al señor consejero primera reunión primera iniciativa del pp discutimos hoy es de octubre el veinticuatro de octubre este grupo parlamentario que represento ahora pidió comparecencia del consejero

en lakua después bildu también solicitó explicaciones en comisión recordando oportunamente

petición del consejero de comparecer a petición propia en la comisión de sanidad termino señalando que nos parece muy oportuna

del plan funcional de álava relacionada efectivamente con un pacto con el grupo parlamentario socialista a eso no le llamaría presión son acuerdos políticos perfectamente defendibles

y que cualquier grupo político que no gobierna con mayoría absoluta normalmente trata de consensuar sus programas para la gestión

por qué no pone en marcha los peajes a las carreteras nada más que señalar de nuevo la necesidad de que el plan funcional

y que en este parlamento como grupos políticos podamos acompañar con aportaciones además
de lo ya modificado nada más y muchas gracias eskerrik asko

suficiente para poder recabar la información la presencia del consejero para que se tramiten las propuestas pero si hace falta o el requisito es apuntarse a las juergas también lo haremos hombre

breve nuestro interés en la sanidad alavesa es elevado y va bastante más allá

que a usted le preocupa fundamentalmente de la sanidad aquí efectivamente

la reunión en lakua de miembros de la comisión de salud y consumo del parlamento vasco no es una reunión de la comisión pero es una reunión de parlamentarios que voluntariamente se acercan a la sede oficial del gobierno vasco a escuchar el plan funcional del hua donde escuchamos cosas le comentamos cosas

nos dijo que si queríamos sugerirle cosas teníamos tiempo

usted pidió el veinticuatro de octubre la comparecencia y lo he dicho antes el método creo que oportuno herramienta parlamentaria para hacerlo pero lo pidió antes de que lo recibiera el consejero el consejero lo recibió el día veintinueve

vamos a aclarar los conceptos usted pidió antes desde el momento en que supo la convocatoria lo pidió lo mismo que hizo la señora garrido en el momento que supo la convocatoria lo pidió

reunión para aprender cosas para debatir cosas no solo se debaten en la sede parlamentaria se pueden debatir en mil foros el pacto entre nosotros y ustedes

se firmó en otro sitio y luego se hizo público realmente

vendrá y vamos a apoyar que sí han aprovechado unos para decir que el consejero ha traicionado la opinión pública y el programa electoral

porque lo saben lo conocen y están opinando sobre él están opinando ya sobre él y sobre el método en que se ha ido gestando y el consejero en aquella reunión de lakua nos explicó cómo lo estaba gestando

con todos los sectores de los hospitales lo explicó o yo estuve escuchando más atento que usted señora roncal

en cualquier caso insisto las cosas de perder poco tiempo es para dedicarles poco tiempo y con esto

sí muchas gracias presidenta buenos días defiendo una iniciativa parlamentaria que fue

una iniciativa parlamentaria que fue registrada el pasado día once de noviembre que fue planteada como urgente y que la mesa

en una decisión que nosotros consideramos absolutamente incomprensible y arbitraria y efectivamente se debate hoy se debate

diecinueve de diciembre cuando ya se han producido decenas de excarcelaciones de presos etarras y

varios homenajes a presos se han producido recepciones a presos de eta que nosotros consideramos que este parlamento debe censurar de manera contundente los objetivos de esta iniciativa son

explicados perfectamente en la iniciativa mostrar nuestra cercanía y solidaridad con las víctimas del terrorismo y comprometernos en hacer respetar los derechos que les asisten instar a la fiscalía a mantenerse vigilante e instar al gobierno vasco

como no podía ser de otra manera a impedir ningún tipo de homenaje a estos presos etarras

los hechos los conocemos todos derogación en nuestra opinión injusta claramente injusta de la aplicación retroactiva de la doctrina parot

una sentencia que evidentemente acatamos como no podía ser de otra manera pero que a nosotros no nos gusta pensamos que ha sido un grave error una grave equivocación pensamos que ha sido una sentencia

injusta y no podemos dejar de recordar por cierto cosa que habitualmente los distintos grupos no recuerdan es que muchos de los beneficios penitenciarios a los que se acogieron los diferentes presos etarras que posteriormente han sido excarcelados muchos de esos beneficios penitenciarios han sido claramente y por lo tanto haciendo una síntesis de lo que ha ocurrido en las últimas décadas nosotros concluimos que es una sentencia injusta y que nosotros por lo tanto públicamente criticamos evidentemente no puede ser lo mismo haber asesinado a una persona

y por lo tanto reiteramos lo que hemos venido diciendo esta sentencia es claramente injusta a partir de esa fecha se

de presos etarras y se produjo el primer homenaje público

a pesar de lo que digan diferentes grupos a pesar de lo que haya dicho el gobierno consideramos que no fue en absoluto una acogida calurosa sino que fue un homenaje e inmediatamente registramos esta iniciativa que como digo la planteamos

y a partir de ahí la decisión incomprensible y arbitraria de la mesa se produjeron posteriormente más excarcelaciones realizamos una pregunta al lehendakari en relación a este asunto el lehendakari negó los hechos y vino a considerar que el asunto no tenía mayor importancia

ante posibles homenajes que pudieran producirse en una actitud que a nosotros nos pareció claramente vergonzosa

atacar incluso a distintos grupos parlamentarios perfectamente democráticos que le plantearon esta cuestión en lugar de decir de manera clara que el gobierno no iba a permitir en ningún caso que hubiera ningún tipo de homenaje en lugar de

y contundente en defensa de la democracia y de la dignidad de las víctimas del terrorismo el lehendakari se equivocó gravemente atacando a varios grupos de esta cámara que le preguntaban sobre la materia hubo más excarcelaciones hubo más

hubo una actitud infame del gobierno vasco que ya digo ataca a los grupos parlamentarios que le piden explicaciones y le piden un compromiso claro en defensa de las víctimas del terrorismo upyd ha denunciado

ante la audiencia nacional pero queremos que este parlamento por dignidad democrática se posicione y le exija al gobierno vasco contundencia

cumplir la ley pensamos que en este caso el silencio no vale pensamos que en este caso

los hechos son extraordinariamente graves debe poder debatirse en este parlamento en abierto sobre estas cuestiones no aceptamos ningún tipo de censura en este parlamento se habla de lo que cada grupo plantea debe haber libertad queremos que de este asunto se hable en abierto

esencial los hechos ya digo son graves estos homenajes suponen enaltecimiento del terrorismo

absolutamente injustos es un insulto inaceptable a las víctimas del terrorismo pero en realidad al conjunto de la sociedad democrática debemos impedirlos el gobierno vasco debe decir que está dispuesto a impedir cualquier tipo de homenaje que se pueda producir

el gobierno vasco y el lehendakari deben mostrar su cercanía hacía las víctimas del terrorismo el gobierno vasco debe decir que va a cumplir la ley y hacer cumplir la ley debe por tanto comprometerse a impedir que pueda haber en el futuro

ningún tipo de homenaje censurarlos criticarlos de manera clara y detener a sus autores pedimos por lo tanto a los grupos que voten a favor de esta iniciativa hay quien ha venido diciendo y es posible que se repita otra vez

sino recepciones calurosas se imaginan ustedes que hubiera un grupo de personas que recibiera con vítores a un violador

la respuesta contundente de todos los grupos de manera unánime de esta cámara evidentemente sí se produciría esa respuesta unánime del conjunto del propio gobierno diciendo que tal hecho es absolutamente inaceptable no vendría a decir ningún consejero que esos vítores que esos aplausos o que esa recepción es una simple recepción calurosa

no solamente el gobierno no solamente todos los consejeros no solamente el lehendakari sino todos los grupos de la cámara nos habríamos unido para decir que es inaceptable

a un violador que pudiera ser excarcelado en fin lo cierto es que el grupo socialista y el grupo popular han presentado sendas enmiendas que nosotros en todo caso respetamos en algún caso efectivamente puede ser

que podamos decir básicamente lo mismo y llegar a un acuerdo transaccional en este caso yo sinceramente creo que lo que debe hacer cada uno de los grupos es defender su enmienda creo que la enmienda del partido popular dice básicamente lo mismo

y la enmienda del grupo socialista añade alguna cuestión más yo le querría decir al grupo socialista que podemos estar básicamente de acuerdo con su enmienda pero que en todo caso aquí no estamos hablando

si efectivamente hay que decir que se acata la sentencia nosotros podemos decirlo

pero en ese caso y si en algún caso se me planteará la firma de alguna transaccional yo añadiría además decir que no estamos de acuerdo con esa sentencia yo añadiría además al hecho de decir que acatamos esa sentencia y que respetamos

no estamos de acuerdo con la sentencia porque nos parece claramente injusta en este caso ya digo que no ha habido ninguna transaccional creo que cada grupo podrá defender

se vea que hay una pluralidad en relación a este asunto entre los diferentes grupos en todo caso no descarto que pudiéramos alcanzar una enmienda de transacción pero para decir básicamente lo importante que en nuestra opinión debe decirse solidaridad y apoyo a las víctimas

instar al gobierno vasco a que cumpla la ley y haga cumplir la ley e instar a la fiscalia a que esté vigilante creo que esto es lo fundamental que los partidos políticos

podríamos acordar la enmienda del partido nacionalista vasco es inaceptable es inasumible porque nos propone

propone silenciar a un parlamento y nosotros no estamos de acuerdo con silenciarnos no estamos de acuerdo con autocensurarnos

este tipo de asuntos para que cada grupo político libremente diga lo que considere necesario de manera abierta en fin acaso no podemos mostrar nuestra cercanía a las víctimas del terrorismo acaso este parlamento no puede mostrar a las víctimas del terrorismo sin necesidad de crear ninguna ponencia creo que debe hacerse así y es lo que nosotros proponemos acaso no puede decir este parlamento

que defendemos y estamos dispuestos a seguir defendiendo los derechos de las víctimas del terrorismo acaso este parlamento no puede censurar los homenajes

o los posibles homenajes que pueda haber en el futuro acaso este parlamento

que no está de acuerdo con esas recepciones calurosas que nosotros consideramos en algunos casos homenajes creo que este parlamento debe decirlo y

que pretende censurar a los grupos de esta cámara o pretende censurar el debate abierto y sin embargo no quiere censurar los homenajes

en fin esto es por lo tanto lo que nosotros proponemos y pido el voto a los grupos políticos democráticos de esta cámara para que voten a favor

una iniciativa que se tendría que haber debatido antes pero que ha llegado ahora quizás sí se hubiera debatido antes habríamos impedido determinados homenajes

señorías yo lamento que no lleguemos a acuerdos en cosas fundamentales y básicas y que además

señor maneiro se deba a matices

pena yo voy aprovechar esta intervención para compartir con ustedes una reflexión ateniéndonos

en un tono constructivo porque yo creo que es lo que debemos hacer en un momento como el actual y

diciendo que las sociedades democráticas avanzadas y modernas se caracterizan por su respeto a la legalidad es cierto

para ordenar la convivencia y permitir que sus ciudadanos puedan desarrollarse en libertad sin más condicionantes o limites que esas mismas reglas autoimpuestas son sociedades

que rechaza la exaltación del terrorismo y a quienes quieren prestigiar o justificar su utilización son

los valores cívicos el respeto a la legalidad y prestigian precisamente aquellos que construyen puentes entre diferentes cimientos sólidos en definitiva de convivencia

azotada por el odio de una minoría de vascos contra el resto de vascos

por el intento sistemático de esa minoría que en el mismo seno de su sociedad decidió no aceptar no acatar no compartir las reglas del juego y alcanzar sus fines con la violencia y la intimidación sistemática hoy esa sociedad antes machacada hoy mira al futuro con optimismo

la sociedad vasca afronta el inmenso reto de recuperarse de tanto odio afronta el reto de superar tantos años de dolor

inmunizado de terrorismo afronta afrontamos el reto de establecer unos cimientos sólidos que garanticen que lo padecido nunca más volverá a suceder

durante largas décadas durante las largas décadas que padeció el terrorismo fue superando progresivamente el miedo con dignidad la inmensa mayoría de vascos y esto hay que repetirlo una y mil veces la inmensa mayoría de vascos

nítida y claramente a la utilización de la violencia terrorista lo hizo en la calle con manifestaciones de solidaridad con las víctimas del terrorismo

apoyando mayoritariamente también a las fuerzas políticas que desde las singularidades propias y desde las discrepancias

estaban estábamos unidos en un principio básico eta no

la respuesta de la banda terrorista eta así como la de quienes desde la política justificaban cuando no aplaudían sus atentados fue siempre y sistemáticamente

dar la espalda a la voluntad mayoritaria de la sociedad vasca eta ignoraba y despreciaba a los vascos como lo sigue haciendo ahora

a dejar de hacerlo a pesar del clamor popular para que lo hiciera y siguieron matando durante demasiados años en nombre del pueblo vasco y con cada asesinato asestaba un mazazo

a nuestra convivencia y a la dignidad de una población en nombre de la cual

cada asesinato de eta iba acompañado además de una justificación por una parte de nuestra población que lejos de condenar o rechazar esos atentados creía y defendía abiertamente que asesinar estaba justificado mientras cada asesinato

obtenía un rechazo abrumadoramente mayoritario del arco político vasco al tiempo recibía una justificación política por parte de la aislada izquierda abertzale hoy derrotada eta

ni conversión democrática por parte de sus miembros sino gracias a la acción y eficacia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado de la justicia y la reacción ciudadana

menos dramáticos porque no hay asesinatos pero tremendamente importantes para nuestro futuro debemos de encontrar el camino que nos lleve a garantizar

cobijo argumento legitimador o justificación aceptada

en euskadi debemos encontrarnos en el acuerdo básico de que eta nunca debió de existir que ni uno solo de los policías guardias civiles

cocineros periodistas jueces taxistas profesores de universidad o niños que fueron

tuvieron justificación alguna debemos encontrarnos en el principio básico que afirma que quienes justificaron desde la política esos asesinatos tuvieron razón se equivocaron hicieron mal y daño a esta sociedad sociedad a la que deben aún una petición sincera de perdón

del daño que nos hicieron debemos de encontrarnos en el principio básico de que en democracia la discrepancia en las ideas la discrepancia en los sentimientos e identidades diferentes no suponen un conflicto

a gestionar permitiendo que puedan convivir y nosotros creemos que así podremos empezar a consolidar los principios básicos sobre los que construir una sociedad vasca como les decía antes

o al menos que rechace el odio una sociedad en cuyo seno no quepa la menor duda de que la violencia y el terrorismo son absolutamente rechazables y por eso el reto al que nos enfrentamos es inmenso

todavía hoy que no comparte estos principios básicos que cree que el asesinato tuvo alguna justificación que era la lucha armada de unos gudaris hay una parte de esta sociedad que cree

era la consecuencia lógica de no pagar el llamado impuesto revolucionario al pueblo vasco hay una parte de esta sociedad aún hoy día que cree y defiende que la amenaza y el insulto al discrepante la quema de autobuses o de contenedores era lucha

y hay una parte de esta sociedad todavía hoy que cuando un terrorista de aquellos quedio la espalda al pueblo vasco

que asesinó en nuestro nombre insultando con cada atentado el buen nombre de los vascos hoy cuando sale a la calle libre tras haber cumplido su condena

está dispuesta quiere jalearle y recibirle en su pueblo como a un héroe y eso insisto

pasa en el seno de nuestra sociedad y cuando el portavoz del gobierno vasco acusa y califica la política penitenciaria

de criminal y de vengativa y dice que quienes jalean a esos que salen de la cárcel después de haber cumplido condena por haber cometido atrocidades son recibidos

van también en dirección contraria de lo que necesitamos porque proyecta un mensaje contrario al que necesitamos

porque no se censura ni se rechaza con contundencia hoy aunque al principio de la intervención del señor maneiro lo pudiera parecer no estamos debatiendo sobre una sentencia dictada en ningún tribunal

porque además entrando en esa senda yo creo que entra usted en una senda preocupante que le equipara

tampoco nos constituimos en tribunal para calificar

nosotros hablamos de política de principios democráticos de cómo nos organizamos cómo nos manifestamos para construir una euskadi mejor sin duda infinitamente mejor

por eso nosotros reclamamos un acuerdo hoy que con hoy que eta no mata entre quienes acordábamos cuando eta asesinaba indubitados sobre principios claros

un liderazgo sobre estos principios básicos

avergonzada y temerosa en el seno de una ponencia sin transparencia por miedo al enfado de la izquierda abertzale o por cálculos interesados que le impiden acordar en público con el partido popular y con el partido socialista y en su defecto con upyd

claro que sí el liderazgo entraña riesgos pero es una obligación de cualquier dirigente político que asume el gobierno de una tierra de un país el liderazgo es inexcusable en público con luz y taquígrafos un liderazgo que consolide principios básicos democráticos sobre todo en una sociedad

no vale esconderse no vale buscar
espacios oscuros en una ponencia sémper jauna joan amaitzen mesedez acabo ya señora presidenta ustedes

señores del partido nacionalista vasco habrán calculado las consecuencias de su estrategia no me cabe la menor duda de esa estrategia que evidencian en su enmienda de hoy solo quiero decirles una cosa para terminar

se hace de un pasado de terror y de quienes lo defienden merece toda la contundencia pública también en el rechazo política

la apología de la democracia necesita también de toda la claridad de toda la transparencia en nuestra sociedad porque solo así podremos empezar a construir un futuro mucho mejor que lo que ha sido nuestro pasado

gracias señora presidenta señor maneiro los socialistas vascos plenamente conscientes

el dolor el sufrimiento incluso la rabia que estos momentos sienten muchas víctimas del terrorismo al ver que

de una decisión de los tribunales como consecuencia de la derogación de la doctrina parot precisamente porque somos plenamente conscientes de ese estado de ánimo

nuestro cariño nuestro respaldo y nuestro apoyo a las víctimas del terrorismo y tampoco tenemos ningún inconveniente así se recoge también en nuestra enmienda

que adopten las medidas necesarias para evitar que se ofenda a las víctimas que se pueda vulnerar la ley en esos

que algunos ex presos etarras condenados por terrorismo y ahora excarcelados reciben cuando llegan a sus domicilios

es evidente que una parte de la sociedad y esto es lo más importante

diciéndole a esos presos etarras que lo que hicieron estaba bien y lo que hicieron estaba mal porque cometieron actos terroristas y por lo tanto siempre están mal cometer actos terroristas y asesinar

además de hacer todo esto insisto en que tenemos que exigir ser todos muy rigurosos con todos los poderes públicos para cumplir la ley especialmente las leyes de apoyo de amparo de reconocimiento a las víctimas del terrorismo nos parece que también es muy buen momento para hacer pedagogía democrática para

en una democracia en un estado de derecho consolidado que es necesario reiterar y defender los valores de la democracia y los principios y que por lo tanto también vivimos en un estado con separación de poderes

las decisiones de los tribunales especialmente también de aquellos tribunales que emiten su decisión referido

fruto de convenios internacionales que hemos aceptado precisamente por ser una democracia consolidada hacer pedagogía democrática y ser exigentes es muy importante eso es lo que contiene la enmienda que nosotros hemos presentados y por lo tanto no tenemos ningún inconveniente en buscar acuerdos

atzera bueltatzen ziren nuestros principios en relación con los planteamientos que establece la proposición no de ley están claros los hemos repetido

en pleno en comisión en ponencia en declaraciones públicas por escrito

por lo tanto no vemos qué se pretende con esta proposición no de ley bueno

avanzar en estos temas queremos caminar hacia delante lo hemos dicho siempre y lo hemos demostrado siempre la solidaridad con las víctimas la posición firme contra eta

sobre la memoria lo hemos dicho y lo hemos elevado al rango más alto que puede elevar una sociedad esas declaraciones al rango de ley

con las víctimas del terrorismo y con el respeto que merecen y con el comportamiento exigido a las administraciones públicas en este sentido ese es nuestro suelo y por mucho que lo repitamos jueves tras jueves impostemos la voz que lo digamos más o menos poéticamente ese es el compromiso y la guía que tiene este partido y este gobierno a este respecto

en la aprobación en el pleno monográfico en esta legislatura por lo tanto no vamos a repetirnos ese es el suelo ético esos son los compromisos del partido nacionalista vasco respecto a la paz y a la convivencia en este país

una prueba del label democrático jueves tras jueves porque ese es el compromiso

recientemente ratificado y proyectado hacia el futuro a través del plan de paz y convivencia aprobado por el gobierno vasco por lo tanto como

esta proposición no de ley no sé si busca pero desde luego no consigue avanzar es el mismo discurso con los mismos ejemplos ya usados todas las semanas el violador

todo esto resuena a algo ya esto sí que es caduco

señor sémper el repetir continuamente el mismo discurso

que no aporta que no gana al contrario repetir continuamente los mismos argumentos los desgasta y nosotros no queremos desgastar esos valores

el valor de la convivencia y el valor de construir una sociedad normalizada no queremos desgastarlos y por eso no vamos a entrar a ese debate

es parlamento también y en la ponencia no se habla con secretismo en la ponencia se avanza se trabaja para poder avanzar y los acuerdos cuando están maduros

o a este pleno como ha sucedido hasta ahora por lo tanto señor sémper

porque somos no este partido sino esta sociedad y este parlamento

los más modernos según su definición que ha hecho hoy

porque no hay un parlamento en el mundo que se haya pronunciado tantas veces

que definen la modernidad no creo que es necesario seguir insistiendo en ellos ya hemos demostrado que en eso también somos los más modernos queremos avanzar

intentando impedir que esta sociedad avance

las exigencias están puestas y no echamos ni un ápice ni un paso atrás al respecto
con memoria está dicho y está ratificado en eso nos ratificamos hoy también nada más gracias eskerrik asko

erasoak se estaba creando un caldo de cultivo un clima

manifestaciones con banderas y saludos fascistas incluidos

que generaban a su vez insultos de trazo grueso y amenazas ustedes lo provocaron y curiosamente ustedes experimentaron sus consecuencias es por eso que desde nuestra coalición ante esa situación se decidió actuar con absoluta responsabilidad en euskal herria se ha actuado con absoluta responsabilidad se ha querido evitar que la vuelta de los presos sometidos a aquella doctrina parot

generase más tensión para los presos para sus familiares y para la sociedad

con más fidelidad algunos términos que se emplean aquí jalear enaltecer cobijar prestigiar justificar homenajear recepciones calurosas porque creo que valen lo mismo para un roto que para un descosido habrá que aclarar términos etéreos vaporosos como humillación dignidad menosprecio que están siempre sometidos a sus interpretaciones apresuradas y de emergencia ustedes están seguros porque así lo han leído en algún periódico que se han producido delitos sin embargo

les desautoriza de sesenta y cinco presos liberados se han presentado cuatro presuntos casos de enaltecimiento tres de los cuales han sido inmediatamente archivados no hay hechos no hay delitos no hay caso por lo tanto no hay debate

el que ustedes hayan traído aquí este tema para lanzarles una pregunta

hay algunas víctimas que manifiestan su deseo de tomarse la justicia por su mano después de ver cómo esa justicia no existe y se ha reído de nosotros son palabras de una

el ranking pero sí al menos rubricadas con la firma de su presidenta ustedes que aseguran que las víctimas siempre tienen la razón que aseguran la proximidad

palabras consideran ustedes también que la justicia no existe de hecho piden en

la actuación diligente de los servicios públicos que se mantengan vigilantes

desde su proximidad a estas víctimas explíquennos si no constituyen una amenaza dígannos quienes pueden ser sus objetivos repito

deseo de tomarse la justicia por su mano después de ver cómo esa justicia existe explíquennos si nos tenemos que preocupar por algo dígannos si están de acuerdo o no con estas palabras y si lo están dígannos qué harán para mitigar ese sentimiento de venganza y evitar que se produzca

las declaraciones antidemocráticas son las suyas son las suyas las actuaciones antidemocráticas son las suyas

las históricas las recientes y las de ahora ahí está su pasado por lo tanto declaraciones antidemocráticas las suyas pasado antidemocrático el suyo vergonzoso apoyo a una banda terrorista este es el resumen de su trayectoria

apoyo expreso y tácito a una banda terrorista no puede haber mayor vergüenza que esa

ultras son ustedes los fascistas son ustedes hablaba de jalear homenajear efectivamente son ustedes los que históricamente en el pasado y en el presente han jaleado han homenajeado y han apoyado a eta

todos los aquí presentes lo sabemos también usted por lo tanto ustedes son los ultras y ustedes son los fascistas ustedes son

históricamente humillar efectivamente a la sociedad democrática ustedes son los que han pretendido humillar a las víctimas del terrorismo víctimas que no han hecho otra cosa que padecer

mejor dicho perfectamente discriminada de eta las víctimas del terrorismo lo único que han hecho ha sido padecerles a ustedes padecerles a eta y padecerles a ustedes y han tenido un comportamiento ejemplar

absoluto al estado de derecho nunca se han tomado la justicia por su mano nunca lo han propuesto y lo único que han hecho ha sido padecer padecer a eta

eso es lo que han hecho las víctimas del terrorismo y la inmensa mayoría de la sociedad y de la democracia padecer a eta y padecer sus insultos padecer su apoyo tácito y expreso a una banda terrorista creo que ya ha llegado el momento de que ustedes pidan perdón

de apoyo tácito y expreso a una banda terrorista por lo demás tengo que decir que me da pena que el partido popular

me equipara con la izquierda abertzale espero que se corrija porque

que acatamos la sentencia del tribunal europeo de derechos humanos pero que nos parece injusta si efectivamente usted no ha dicho eso lo retiro no hay ningún problema pero tengo anotado

respetamos las sentencias de los tribunales las acatamos pero también digo muy abiertamente porque además se puede decir en democracia que la sentencia del tribunal europeo

no la compartimos y nos parece claramente injusta respeto por lo demás en relación a la posición socialista evidentemente respeto

la sentencia no nos gusta y si ustedes están dispuestos a incluir en un punto

nosotros estaríamos dispuestos a firmar una transaccional de ese tipo

lo que ha dicho el señor ares independientemente de que haya delito se ha trasladado un mensaje de apoyo en muchas ocasiones a quienes cometieron

de ello me parece correcto y estoy de acuerdo con eso y el señor iturrate ha venido a preguntar permanentemente por qué y para qué esta iniciativa porque las excarcelaciones masivas de presos etarras se han producido en las últimas semanas

y por lo tanto puesto que nosotros pensamos que merecemos un parlamento nos parece fundamental que este parlamento vuelva a decir

que no estamos de acuerdo con esos homenajes y nos parece razonable que pidamos al gobierno que efectivamente se comprometa a impedir cualquier tipo de homenaje siempre

a las víctimas del terrorismo por qué no una vez más ya digo porque además las excarcelaciones se han producido ahora y los homenajes se han producido ahora y por lo tanto pensamos nosotros que más que el silencio

posicionarse de manera clara y contundente votando nuestra iniciativa o votando las enmiendas si quieren ustedes del grupo popular y del grupo

leyendo un párrafo de un artículo escrito por santiago gonzález hace apenas dos semanas decía así la recepción

deben ser una manera de compadecer la consejera y el portavoz deberían ver el testimonio del guardia antonio moreno

la víctima de la bomba que el de usansolo había puesto dentro de su coche

creerá el portavoz erkoreka que un pasillo con antorchas

para los padres del niño fabio moreno asla efectivamente humillación insoportable y puesto que queremos un gobierno digno y un parlamento digno queremos que este parlamento se posicione a favor de las víctimas del terrorismo

creo que su referencia a las víctimas del terrorismo en cierto tono burlón con esto de los rankings y tal me parece inaceptable pero no me voy a detener en eso me voy a detener sobre algo que usted ha manifestado que me parece también importantísimo sobre la justicia por la mano y todas estas cosas usted es padre o tiene hermanos o es hijo muchos de ustedes serán padres tendrán hijos

javi de usansolo puso una bomba en un coche y asesino un niño de tres años el crudo relato que ha hecho el señor maneiro es muy acertado multiplíquele eso por

cruel historia de eta ni una sola de las víctimas

o con un coche bomba ni uno solo de los hijos que vio y que padeció

nunca la justicia por su mano por cruel por terrible

por extremo que hubiera sido el dolor padecido nunca nadie nadie se ha tomado

por su mano y las víctimas del terrorismo y la inmensa mayoría de la sociedad democrática lo único que pedimos ahora una vez derrotada eta es respeto respeto reconocimiento

no solo las víctimas del terrorismo que por supuesto también que fueron quienes pagaron con sangre

respeto y perdón a la sociedad vasca en nombre de la cual eta cometió esas atrocidades

la cual ustedes justificaron esas atrocidades eso es lo que estamos reclamando el liderazgo que le reclamamos al lehendakari que le reclamamos al señor iturrate al partido nacionalista vasco señor iturrate

que no aparece ese debate que ustedes quieren llevar como decía usted a un ámbito protegido

a una parte de la población vasca que cree que todo ese relato que el relato de la cruel existencia de eta tuvo alguna justificación que se permite el lujo de salir a esta tribuna y alertar sobre el posible consecuencias o venganzas de quienes nunca lo han hecho

este país necesita una apología continua de la democracia este país necesita que sus instituciones que su lehendakari que el principal partido de euskadi lidere la regeneración democrática en esta tierra que lidere junto con el partido socialista y con el partido popular

un mensaje nítido y claro a esta población y a esta sociedad que necesita esos mensajes

a un ámbito protegido ha dicho ustedes pretenden que vivamos de espaldas a una realidad que se está produciendo y es que hay una parte de esta sociedad

que tienen esos discursos y es importante que hagamos pedagogía democrática claro que es importante que lo hagamos en esta cámara claro que a lo largo de la historia ha habido muchas ponencias pero cuándo una ponencia a hurtado el debate en esta cámara señor iturrate cuándo

ha impedido que en esta cámara debatiéramos votáramos lo que fuera sobre esa materia ahora porque el partido nacionalista vasco quiere hurtar el debate en esta cámara

por una cuestión simplemente de interés electoral de disputa con la izquierda abertzale ustedes no quieren sacarse la foto con el partido popular y con el partido socialista aunque sea eso lo que necesite la sociedad vasca

en relación a estos señores pero tampoco les conviene la foto con estos señores porque quieren jugar esa especie de situación intermedia de equilibrio entre posturas radicales mire señor iturrate en la defensa de los principios democráticos hay que ser radical

en decir que el asesinato o el terrorismo nunca tuvo justificación

un pasado de terror claro que sí eso no hay que llevarlo a ámbitos protegidos

tenemos que acordar tenemos que liderar conjuntamente esta euskadi post eta hemos superado lo más complicado

lo hemos conseguido ahora vamos a ser incapaces de acordar en el después de eta el liderazgo democrático de la sociedad vasca juntos de verdad que tenemos que lleva a una ponencia parlamentaria

decir que está mal javi de usansolo tu lucha es nuestro ejemplo que es lo que rezaban las pancartas cuando recibieron a javi de usansolo asesino de un niño de tres años

un ámbito protegido no podemos acordar los tres más upyd eso aquí

que desde la firmeza democrática de los principios básicos que da hasta vergüenza repetirlos de lo lógicos que son es verdad

a qué tienen miedo qué quieren ocultar por qué no se suman a la reivindicación necesaria legítima que tiene esta sociedad y borrar una vez por todas el discurso legitimador de quien dijo asesinar en su nombre

quienes creen que la violencia tuvo alguna justificación no puedan tener la tentación sí señor arzuaga de volver a utilizar las armas para defender nada

referido a unas presuntas declaraciones sobre alguien que hablaba de la venganza o

para que quede clara la posición de los socialistas lo compartimos y rechazamos estamos en contra de ese tipo de comportamiento y de ese tipo de declaraciones como estamos en contra rechazamos repudiamos condenamos

por supuesto también todos los actos terroristas que ha cometido eta incluido los muchos asesinatos que ha cometido en esta sociedad

de que algunas cosas que están ocurriendo se llamen como se llamen en el fondo se está lanzando un mensaje de justificación

o se les estaba dando un mensaje de que eso está bien cuando está radicalmente mal seguramente eso será

el día que hagan todo eso estos señores ese es el camino mejor para poder avanzar

le rogaría que se leyera con un poquito más de calma nuestra enmienda pero en todo caso

reiterar principios defenderlos votarlos que refugiarse en la defensa de instrumentos que ya se han demostrado que no son útiles y que

más contundentemente por eso creo que hay momentos en los que uno

si refugiarse en defender instrumentos o aunque sea reiterar defender votar y apoyar principios y valores

debería primar la defensa de esos valores aunque sea reiterarlos en la defensa de instrumentos que no son útiles

no se trata señor ares de defender instrumentos se trata de defender la efectividad se trata de avanzar se trata de conseguir acuerdos

un mismo argumento porque por mucho que repitamos las cosas lo decía en mi primera intervención por el hecho de repetirlas

avanzar al contrario acabamos manoseando y banalizando las declaraciones

y eso es a lo que no queremos participar hasta ahora señor ares ustedes tampoco querían participar y en la legislatura pasada mantuvieron el mismo planteamiento

y ustedes también mantuvieron ese planteamiento en marzo

y todavía no nos ha explicado ni usted ni el partido socialista qué ha sucedido desde el mes de junio del año pasado hasta ahora qué ha cambiado en este país a peor en qué hemos retrocedido para que el instrumento que ustedes con nosotros consideraban fundamental

no lo sea en este momento quizá los instrumentos señor ares

cuando usted tiene la pelota cuando usted es el que marca las reglas del juego cuando usted está en el gobierno y no cuando está en la oposición

la razón que le lleva a tomar esa decisión en todo caso usted sabe perfectamente

personalmente del compromiso de este partido del lehendakari y de todos sus miembros

en este país sabe de la lealtad con que este partido ha actuado cuando está en el gobierno

usted en el gobierno por lo tanto no pretenda desdibujar

a este respecto tenemos que acordar planteaba el señor

dónde se acuerda la unilateralidad es una vía para el acuerdo es un buen procedimiento para el acuerdo la sobreactuación el esperpento la acusación permanente es una vía para el acuerdo hasta donde yo sé cada acuerdo que hemos alcanzado es porque hemos hablado primero todos los acuerdos el último

fue fruto de conversaciones todos los acuerdos que ha alcanzado este grupo con el suyo con aquel con cualquier otro grupo son fruto de las conversaciones del trabajo previo y no del brindis al sol no de la sobreactuación porque a qué venimos aquí

venimos a hablar de eso o venimos a decir al lehendakari a acusar de indignidad del lehendakari a acusar de falta de acción del lehendakari sí sí usted y el señor maneiro a qué hemos venido nosotros hemos dicho

en público y en privado en este parlamento y fuera de este parlamento que esas actuaciones son indignas que están fuera de la ley y cuáles son las base sobre las que tenemos que construir la paz en este país que no pasan por admitir ese tipo de comportamientos pero ustedes han venido aquí

a escenificar han venido a sobreactuar y en eso no van a contar con este partido porque buscamos avanzar porque buscamos el respeto a los derechos humanos para todo el mundo y en todas partes en todas las situaciones también para aquellas personas que han cumplido su condena y tienen derecho a salir de la cárcel

el reproche moral a quien ha cometido atentados como los que ha cometido

entendible es justificable incluso pero no todas las actuaciones que se producen para expresar ese rechazo moral son justificables

una y mil veces y lo seguiremos haciendo pero no queremos sobreactuar no queremos manosear queremos avanzar y como para lograr acuerdos hay que esforzarse hay que trabajar hay que hablar eso es lo que proponemos que nos esforcemos todos

señor ares me emplaza a decir lo mismo que dice usted

yo tengo otra formulación ninguna violencia ninguna imposición lo hablamos

a una formulación conjunta señores de upyd y del pp el problema no está en la calle no está en usansolo no está en legazpi no está en bilbo no está en laudio el problema lo tienen ustedes

una alarma social que realmente no existe para que tenga además consecuencias indeseadas azuzaron sentimientos que llevan a expectativas irreales

señor sémper me dice no se ha tomado nunca la justicia por su mano no se ha operado nunca al margen del estado nunca jamás

del estado de los límites de lo que ustedes consideran un estado de derecho nunca jamás

no lo reconocen ustedes provocaron este problema ustedes

el fuego por sus intereses y sus prioridades y tienen ustedes la mayor responsabilidad

enfrentarlo no como lo están haciendo ahora con gasolina esan nezake presoak ez direla euren

el dolor el sufrimiento de ciertas víctimas y le digo que lo hago mío hay una diferencia y es que usted no lo hará con otras víctimas

hoy mismo hace diez años josé atanes

beasain fue muerto por un ertzaina cuando fue confundido presuntamente con ser un miembro de eta esta persona está reconocida esta persona

reparados tiene la verdad tiene la justicia tiene toda la memoria mire señor sémper hablemos de todo hablemos de todos

o si seguimos seguimos para acabar porque sino es lo mismo de hecho

lau helegite ipini diren eta bakar batean hartu den aintzat en total ha incoado más de setenta y cuatro contenciosos en los tribunales

por supuestas exaltaciones del terrorismo se ha puesto las gafas de ver actos de terror en cualquier actuación o expresión

antítesis del respeto democrático en numerosas ocasiones ha traspasado ampliamente la línea del ridículo pero lo más grave es que su actuación es un menosprecio a las decisiones de los representantes ciudadanos

institución ni siquiera su persona ha sido elegido por mecanismos democráticos nadie le ha votado la institución que representa no se somete a ningún proceso electoral y pretende qué es lo que deben hacer aquellas instituciones y aquellas personas que ostentan su cargo como consecuencia de un proceso electoral democrático

presidenta vamos a ver qué es lo que dice la justificación de eh bildu eh bildu señala que los delegados del gobierno de españa han mantenido históricamente una intromisión injusta en el debate y la actuación política

los define como figura que responde a prioridades y necesidades que son extrañas a este país y cuyo nombramiento hace caso omiso a lo decidido democráticamente

para eh bildu todos los que no somos ellos es decir ustedes o al menos

somos ajenos y extraños a este país esta es la realidad lo digan de manera bronca o lo digan de manera más dulce realmente eh bildu es esto todo lo que no somos ellos

tenemos que irnos de euskadi y lo plantea y extiende este principio también a la justificación de esta iniciativa ehb al actual delegado del gobierno carlos urquijo una intromisión política ilegítima y le acusa de violaciones arbitrarias de los derechos fundamentales de opinión expresión y asociación y de nada menos que vulnerar los derechos civiles y políticos básicos de las personas

vulnerando los derechos civiles y políticos básicos de las personas es decir eh bildu

constitucional ilegal como la del delegado de gobierno justo aquello que ha sido el adn de la trayectoria proetarra de la izquierda

y acusa a carlos urquijo justo de lo que ha sido

a saber violaciones arbitrarias de los derechos fundamentales de opinión

y asociación y vulneraciones de los derechos civiles y políticos básicos de las personas yo cuando leí la iniciativa pensaba que ustedes estaban hablando de ustedes mismos en fin todas estas son un cúmulo de acusaciones absurdas y disparatadas tan habituales en el mundo de la izquierda abertzale efectivamente las actuaciones a las que se refiere eh bildu son la elección de la txupinera en las fiestas de bilbao jone artola vinculada con etxerat y del pregonero de las fiestas de llodio pablo gorostiaga que fue

por la delegación del gobierno entre otras serie de actuaciones que nosotros apoyamos

con el objetivo de exaltar a los etarras y exaltar el terrorismo por lo tanto lo que ha hecho el señor urquijo es tratar de evitar esos actos que suponían vulneración de los derechos fundamentales y que suponían un insulto evidente a las víctimas del terrorismo y a la sociedad termina con otra mentira que pretende asentar

dar pasos para impulsar la normalización la paz y la convivencia precisamente algo que nunca ha hecho

dar pasos para impulsar la normalización la paz y la convivencia la misma izquierda

y a exigir su disolución definitiva e incondicional evidentemente apoyar o justificar las acciones criminales de eta no parece que sea dar pasos

todo lo contrario pero lo cierto es que de ese modo tal y como ha venido haciendo durante los últimos meses lo que eh bildu pretende es blanquear ustedes pretenden blanquear

de apoyo a eta pero evidentemente no cuela en fin yo podría dar además una serie de razones constitucionales jurídicas e incluso competenciales para decir que en nuestra opinión la figura del delegado de gobierno debe mantenerse porque nos parece apropiada en la españa constitucional actual

y en fin ya digo dar una serie de argumentos jurídicos razones competenciales de toda índole para defender que nosotros

que lo planteara de esta forma y que explicará cuáles son las razones competenciales por las cuales esta figura en concreto sobra pero es evidente que es imposible hacerlo

no democrático como eh bildu es imposible porque además todas sus iniciativas no solamente es que estén contaminadas es que están regadas con falsedades mentiras

constitucional y necesaria en nuestra opinión obviamente eh bildu pretende desmantelar el estado

en contra de su iniciativa eh bildu pretende suprimirlo todo y que nos vayamos todos los que no pensamos como ellos

de su pensamiento y el resumen de la trayectoria de la izquierda abertzale

todos somos extraños todos somos ajenos a euskadi y por lo tanto todos debemos irnos antes lo impulsaron defendiendo el terrorismo de eta y ahora lo plantean con determinadas iniciativas que están por otro lado plagadas de mentiras y de cinismo

va en esa línea es una más de tantas planteadas y debatidas durante esta

sé si física del delegado pero en realidad lo que está pidiendo es que se vaya la guardia civil que se vaya la policía nacional que se vaya todo lo que venga de españa porque todo esto es lo que a ustedes

en un debate no excesivamente lejano que nosotros pensamos que la guardia civil y la policía nacional son de aquí deben quedarse

en fin lo que pretenden es por lo tanto es laminar cualquier vestigio y presencia de españa en el país vasco

focalicen esta idea en la figura del delegado pretenden atacar a españa pretenden que nos vayamos todos los que tenemos algún nexo de unión con españa

que trata de defender ese principio máximo del nacionalismo todo lo que viene de españa es malo

del nacionalismo vasco votaremos obviamente en contra eskerrik asko maneiro jauna

gracias señora presidenta buenos días

debatimos hoy una proposición que lo que pide

después de oír aquí apelaciones a ser proactivos constructivos

apelaciones al nuevo tiempo vemos que esas apelaciones la nueva cronología son absolutamente simétricas a los planteamientos propios de quien ha hecho la iniciativa decimos porque esta proposición tanto en el contenido como en la terminología lo que resuma es una absoluto continuismo

y al léxico político utilizado históricamente por todo el entorno de batasuna y de sus posteriores marcas podemos decir que esta iniciativa se podía haber firmado por cualquiera de los representantes de batasuna pero es que es más

firmó una muy similar la intervención de defensa de esa iniciativa

cambió en el tono pero lo que dijo la señora goirizelaia y lo que hoy usted ha dicho aquí es absolutamente

ustedes y su formación política son los únicos que se mantienen anclados encorsetados y presos de su propio pasado

que han sido incapaces de avanzar en sus posiciones políticas pero sobre todo de progresar en sus planteamientos éticos

para romper amarras con el legado de eta y construir un futuro basado en la dignidad en la memoria y en la justicia son los únicos

un proyecto político que reconozca la pluralidad y la diversidad de nuestra sociedad y son los únicos que han demostrado una nula voluntad de reconocer a fecha de hoy

del daño causado por el terrorismo de eta y de condenar su actividad asesina por tanto ustedes representan en la actualidad

y han demostrado una cobardía política impropia de esa sociedad como le decía a la que tantas

realiza una serie de afirmaciones sin ningún tipo de rigor sobre determinadas figuras históricas que nos gustaría matizar aunque sea de forma breve

en la proposición que firmaba y usted hoy aquí ha hablado de la figura del virrey he de decirle que esa figura no fue utilizada aunque no

existió en los territorios que hoy forman euskadi en contra de lo que ustedes pretenden transmitir en esos territorios siempre ha existido una representación

y podemos remontarnos a la figura del corregidor real que era el representante del monarca en nuestra provincia y que tenía funciones tan notorias como presidir la diputación general

sobre mi territorio histórico que pone de manifiesto las vinculaciones históricas que ustedes pretenden manipular

propiedad de la familia don gonzalo moro primer corregidor real de bizkaia donde previamente se encontraba la iglesia curadera en el salón de plenos del mismo

y podríamos poner decenas de ejemplos similares que ponen de manifiesto los estrechos lazos históricos entre los territorios que conforman españa y los que conforman euskadi por tanto les pedimos que si hacen apelaciones históricas lo hagan con más rigor y menos manipulación

como ya se ha dicho aquí la figura del delegado del gobierno está constitucionalmente reconocida

es una figura votada directamente por el conjunto de la ciudadanía vasca que de forma mayoritaria y sobre todo democrática

sus funciones están establecidas en la ley seis barra noventa y siete

vuelven ustedes nuevamente a mostrar su vertiente más radical y manipuladora en su proposición

el carácter legítimo y democrático del actual estatus jurídico político de euskadi

ustedes que tanto dicen defender el derecho a decidir de los vascos

dotarnos de un marco de autogobierno que nos ha permitido a pesar de eta crecer y desarrollarnos como sociedad alcanzando altas cotas de bienestar social

la delegación de gobierno y tampoco lo que representa sino más bien a quién representa

español porque su problema fundamental su problema de fondo

euskadi y españa por lazos históricos por lazos culturales

por siglos de historia compartida euskadi desde la puesta en valor de nuestras singularidades

no puede desligarse de ese proyecto común que es españa

autogobierno ha contribuido y contribuye en primera persona a la cohesión y vertebración de nuestro país

pasada presente y futura de euskadi nos necesitamos mutuamente porque juntos sumamos

y si somos capaces de remar de forma compasada en la misma dirección quien

queremos mirar al futuro sí pero queremos construir un futuro desde la unión

y brindar a la sociedad vasca una oportunidad forjada desde la unión de sensibilidades

ustedes además del problema territorial que no lo admiten tienen un problema añadido

en los pilares básicos en los que se asientan las democracias avanzadas pilares elementales que para cualquier demócrata que se precie

a ustedes les sobra la ley a ustedes les sobra todo les sobran los resortes legales dirigidos al cumplimiento de la legalidad y eso es lo que no les gusta

les sobran los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y les sobra la propia

ustedes lo que quieren establecer un cordón sanitario que les suponga un blindaje jurídico frente a sus reiterados incumplimientos legales

y a quien quiera impedírselo lo censuran lo que no vamos a aceptar tampoco es esa pretensión de establecer un código penal abertzale en la que el enaltecimiento del terrorismo es tipificado como un acto caluroso de acogida

político en el que los secuestros son contemplados como privaciones temporales de libertad o retenciones coyunturales o en la que la extorsión venga reconocida

y en el que las condenas se pueden sustituir por simples lamentos pretenden ustedes en definitiva sustituir legalidad por impunidad dotándose de una serie de eximentes que solo se lo da su simple condición

voy a terminar mi intervención aunque me de pudor porque voy a defender a quien fue compañero mío en esta cámara pero que dado que usted se ha referido a él en términos

voy a defender la figura de carlos urquijo que en todos los años de trayectoria ha demostrado

con los principios y valores de la democracia y con la lucha contra el terrorismo

mantener una actitud de tolerancia cero contra todos aquellos que pretenden vulnerar nuestro sistema legal mire señora mintegi que ustedes presenten una iniciativa reprochando la actitud de carlos urquijo nos tranquiliza ya que ello es la mejor garantía de que sus decisiones

tienen ustedes todavía mucho camino por recorrer mucho necesitan transitar y avanzar de forma decidida en sus planteamientos éticos necesitan recorrer el camino que les acerque a la democracia y necesitan deshacerse de sus déficit y de sus carencias democráticas y necesitan abandonar

que ese camino lo tienen que hacer ustedes en solitario porque están solos que no busquen culpas o responsabilidades exteriores que miren

que reconozcan sus errores y el daño causado porque la sociedad vasca ha iniciado un camino de no retorno hacia tiempos pasados a los que lamentablemente ustedes

a este debate porque sinceramente creemos que no lo tiene no da para más lo que han traído ustedes asistimos a uno de esos debates recurrentes que la coalición bildu nos trae de vez en cuando principalmente con el objetivo de coger al pnv con el día y con el pie cambiado

a costa eso sí de hacernos perder el tiempo a todos en un país que no está precisamente para muchos juegos y además porque ya sabemos lo que da de sí este tipo de estrategias

y para qué sirvió pues para que nacionalistas de uno y otro signo se tirasen los santos a la cabeza descubrimos un pnv que empujaba con fervor al patrón de españa como representante de la fiesta de los vascos y a ustedes acogiéndose al patronazgo de san francisco javier

que no era precisamente un rojo y ahora los señores de bildu nos vienen con otra ocurrencia y es que el gobierno el gobierno vasco asuma todas las competencias del estado que se desarrollan a través de la delegación de gobierno y nos insta no sabemos muy bien a quien a que desaparezca esta figura

de creatividad jurídica porque parece que ha tenido que llegar bildu a este parlamento para que todos nos enteremos que se puede abolir la figura

cosa harto curioso algo por cierto que la constitución tiene claramente definido pero es verdad que de una tacada con lo que ustedes proponen pues

y los vascos asumimos todas las competencias del estado y de paso ensanchamos el ámbito vasco de decisión aunque creo que eso tiene algún problema porque vamos a sobrecargar de trabajo al gobierno del lehendakari urkullu que bastante tiene con lo que tiene para meterse

y a ver de qué van a vivir estos señores en los próximos años en fin todo esto es broma

de pequeña broma y porque independientemente de la valoración que nos merezca la figura del actual

evidentemente vamos a votar en contra de su proposición eskerrik asko pastor jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den egibar jaunak dauka hitza

que realmente no todo lo que viene de españa es malo se me ocurren bastantes cosas buenas lo que no es de recibo es que se sitúe siempre dos peldaños por encima y no se avenga a hablar en igualdad de condiciones en cualquier terreno en terreno de la política de la economía

el caso en que pone una institución que se cree que es superior a instituciones democráticas elegidas en procesos electorales y que tiene

licenciada en historia pero realmente sí ha habido virreinatos y en concreto

es decir que me ha interesado mucho su clase de historia repasaré mis apuntes de la carrera y si tengo que modificar algo lo modificaré pero no es cierto lo que ha comentado

que se tome en cuenta no solo datos históricos sino también conceptos metafóricos las dos cosas que creo que es interesante de asumir

a todos aquellos grupos que han mencionado a la constitución efectivamente

en el artículo ciento cincuenta y cuatro y le dedica dos líneas y media que son exactamente estas

la administración del estado en el territorio de la comunidad autónoma y la coordinará cuando proceda con la administración propia de la comunidad punto no hay más qué es lo realmente grave de lo que dice la constitución sobre el delegado del gobierno

ciento cincuenta y cuatro es decir el preludio el artículo previo al ciento cincuenta y cinco que como todos ustedes saben

cada vez que hay un proceso soberanista para amenazar

con la ruptura o con el cese del estado de autonomía

una y otra vez hoy en día porque es el artículo por el cual se está planteando si se puede dejar en suspenso

soberanista el artículo ciento cincuenta y cinco que se esgrimía hace ocho años cuando el plan ibarretxe planteaba que podía plantearse un proceso soberanista y es precisamente el artículo siguiente al que viene después de la figura del delegado del gobierno

cuando se está planteando que el estado jacobino pueda recuperar sus competencias que actualmente está imponiendo una a una con un tanteo continuo y de paso aprovecho para responderle

gracias de nuevo señora presidenta señora mintegi de verdad que una

de sorprenderse por algunas de las afirmaciones que usted ha hecho aquí

pero sí le digo que euskadi está formado por tres territorios históricos

gipuzkoa y álava en ninguno de los tres ha existido nunca un virrey

no es euskadi segundo usted desde luego yo cuando estudié la carrera en derecho constitucional tengo que decirle que he aprendido algo hoy aquí porque de verdad que me ha dado una visión de la constitución que yo no la tenía de verdad yo eso de que el ciento cincuenta y cuatro que regula la figura del delegado del gobierno esté dentro del ciento cincuenta y cinco por esa especie de teoría de la conspiración

esa teoría de la conspiración de colocamos primero en el ciento cincuenta y cuatro al delegado del gobierno por si hay que aplicar el ciento cincuenta y cinco de verdad

eso sí que es interpretar la constitución y luego ya debe ser también un concepto metafórico

el virrey era un concepto metafórico debe ser el mismo concepto metafórico que usted ha utilizado para hablar de españa como un estado jacobino de verdad

se ha empezado a

para no oír a ninguna de las cuestiones que yo le he planteado en mi iniciativa

porque siguen ustedes estando como le he dicho en el pasado porque los únicos de esta cámara que no miran al futuro son

ustedes sabe por qué les molesta el delegado del gobierno

porque si las competencias que el delegado del gobierno asume que luego le diré

las asumiesen aquí y les obligasen a cumplir la ley

dirían que están provocando como dicen ustedes de la ertzaintza

intenta imponer la legalidad porque llevan demasiado tiempo y aún siguen protegiendo a quienes

y eso es lo que les molesta del delegado del gobierno como les molesta de cualquier gobierno de cualquiera y yo con relación

están en el estatuto y en la constitución

proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades garantizar la seguridad ciudadana

y velar por el cumplimiento de las competencias atribuidas constitucionalmente al estado

ustedes están en el congreso de los diputados si con estas competencias no están de acuerdo es tan fácil como que hagan una propuesta para que se modifique esta ley

pero si es que le voy a decir una cosa

del estado si la máxima representación del estado en euskadi es el señor lehendakari

que se identifiquen a las figuras a quien manda aquí

para que eso también desaparezca y luego que no se elige democráticamente

del gobierno vasco en bizkaia en álava los somete a plebiscito popular o sea

a consultarlo a la ciudadanía y lo mismo vale para bildu

guipuzcoana y dijo les parece bien hay una serie de procedimientos establecidos para elegirlo y hay a quien elige directamente la ciudadanía

hacen otra serie de elecciones pero es que eso sí que es de primero de carrera de derecho pero miren aquí

todo eso son artificios a unos y a otros a ustedes no les interesa mucho despegarse por eso van a votar los dos primeros que sí y el último que no y a los dos lo que le fastidia profundamente

es que euskadi forma parte de españa y que por lo tanto un delegado del gobierno de españa tiene perfecta legitimidad estatutaria y constitucional

a la ponencia de paz y convivencia pues casi casi porque evidentemente vamos a tener que analizar

una memoria sólida no parcial

y ahí ha habido un componente político evidentemente si

cabalmente suficientemente el estatuto de autonomía las competencias que el estado tuviera en la comunidad sería muchísimo menos

si hablamos en concreto de la adecuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado de la adecuación conforme a la previsión estatutaria evidentemente no tendría el señor urquijo en este momento otros con anterioridad

ese nivel de exhibición que está haciendo con la guardia civil por todas las carreteras de la comunidad autónoma

exhibición exhibición no admitiendo la adecuación
isiltasuna mesedez por lo tanto no revisamos

a la delegación del gobierno de españa en euskadi de esa

una mera oficina coordinadora no es algo más es una delegación política

tiene que recomponer dice que va a repensar la estructura territorial del estado pues bueno sería que aprovecharan y hacer que aquellas naciones que no teniendo esa estructura de estado

de estructurarse como comunidad política

un diálogo con aquellas nacionalidades históricas que pretendan hacer ese recorrido está entendido otra cosa es que lo queráis hacer esa es otra cuestión

entonces la figura del delegado del gobierno español en euskadi ha tenido desde el primer nombramiento hasta el último desde luego una caracterización política innegable legítima pero tenemos también perfecto derecho a valorar en perspectiva incluso histórica

del gobierno español en euskadi en las últimas décadas y lo vamos a abordar cuando toque
en la ponencia si viene eskerrik asko egibar jauna